a estas alturas quién no ha oído hablar en euskadi de las aportaciones financieras subordinadas de eroski y fagor y de la situación que padecen aproximadamente unas cuarenta mil personas afectadas que se sienten engañadas

ante la imposibilidad de recuperar su inversión de recuperar en definitiva su dinero señorías estarán de acuerdo conmigo en considerar este asunto como un problema grave con muchas irregularidades y en definitiva sin salida en el que se encuentran atrapadas demasiadas personas las aportaciones financieras subordinadas vinieron a este mundo

y para ser más exacta gracias al artículo cincuenta y siete punto cinco que la regula

utilizar este instrumento para capitalizar las cooperativas por lo tanto las aportaciones financieras subordinadas nacieron

y en este parlamento de aquellos polvos estos lodos

que emana de una ley aprobada en este parlamento y que se ha convertido en una trampa para miles de ahorradores que creían haber adquirido un producto con liquidez asegurada y que sin embargo ahora se encuentran con la imposibilidad de recuperar su inversión

la verdad los socialistas vascos planteamos la derogación del artículo que dio vida a las aportaciones financieras subordinadas y lo hacemos básicamente por tres razones primero porque la práctica y el tiempo nos está demostrando que es una figura con grandes segundo porque los tribunales están anulando vía sentencias previsiones amparadas por las leyes como la que nos ocupa y tercero porque su uso ha generado un problema a las cooperativas y a miles de personas afectadas

y tampoco que se haya comercializado de forma lesiva cuestionamos la razón de ser de una previsión legal

y para las personas afectadas las propias cooperativas reconocieron en su comparecencia en este parlamento que hoy en día no utilizarían esta vía entonces pregunto para qué queremos esta previsión si los tribunales están dejando sin efectos la cobertura legal de esta figura de qué sirve mantenerla el gobierno al emitir su opinión contraria a la toma en consideración de la derogación del artículo cincuenta y siete punto cinco

entre la regulación societaria de la financiación subordinada y la comercialización y nos dice que por tanto no es un problema de ley sino de consumo sin embargo el informe emitido en el año dos mil cuatro por la asesoría jurídica de mil doscientos y que elaboró

dice que lo que se pretendía era reforzar el capital social de las cooperativas

una redacción de la ley totalmente favorable a las cooperativas reteniendo el dinero a perpetuidad y que en caso de cierre de las cooperativas las personas afectadas serán las últimas en cobrar es tan solo un problema de consumo está claro que para llegar a ser consumo primero fue ley entiendo que es una argumentación pobre que bajo nuestro entender no justifica

la no derogación de este artículo el gobierno vasco asimismo

esto sin embargo entra en contradicción con lo que apuntó la directora de kontsumobide elena unzueta recientemente en este parlamento en comparecencia

el gobierno vasco alude para no tomar en consideración nuestra propuesta

ha servido para financiar la necesaria expansión de la actividad cooperativa y con ello el mantenimiento y la creación de los puestos de trabajo y partiendo de la base que sí que esta fue la intención inicial no lo dudamos

la política de expansión llevada a cabo con esta fórmula de financiación y si realmente el efecto ha sido el contrario por ejemplo si analizamos la expansión de eroski

pues señorías ustedes me dirán si es un argumento que se cae por su propio peso no voy a decir más

asimismo argumentar que es la única forma de acceder a capital ajeno al de los propios socios no se corresponde con la realidad porque las cooperativas han utilizado

u otras con mayor o menor riesgo de hecho esta es una de las posibilidades que podrían dar salida al problema generado pudiera ser

el gobierno también argumenta que la derogación del artículo cinco punto siete impediría que en el futuro se pudiera usar este mecanismo

con los complementos añade de información pertinente qué contradicción y precisamente esto es lo que se trata de evitar que situaciones tan despreciables por su contenido y volumen de gente que afectan se puedan repetir acaso

previamente aportando la información debida en su momento proponemos por tanto que aunque el gobierno se haya comprometido en una reforma más amplia de la ley de cooperativas eliminemos de forma inmediata una previsión que deja la puerta abierta a prácticas que están siendo condenadas por los tribunales procede apuntar que en junio de dos mil doce el tribunal de justicia de la unión

en todas y cada una de las actuaciones futuras habló

y que resolvía precisamente una cuestión que está en el fondo del caso que estamos hablando establece que aunque la legislación nacional

a la que se pueda acoger las prestaciones de servicios y las firmas de contratos en la defensa de los consumidores debe prevalecer la directiva europea del año noventa y tres

para proteger al consumidor hay sentencias judiciales en donde los jueces que no pueden por sí anular las cláusulas previstas en las leyes nacionales

las cláusulas abusivas para los consumidores es decir

entre previsión legal y comercialización que argumenta el gobierno

a tal punto se diluye que son ya unas cuantas sentencias dictadas en españa también por los jueces vascos que de forma generalizada

esta cámara ya se ha pronunciado de forma clara en contra de las figuras financieras abusivas para los consumidores también en contra de las llamadas preferentes cuya regulación depende de instancias ajenas

está en nuestra mano no solo mostrar nuestra opinión sino evitar

casos como los que estamos intentando solucionar

porque está claro que se hace necesario introducir nuevas fórmulas de financiación

de que eso va a significar el fin de las aportaciones financieras subordinadas porque entre otras cosas va a ser una consecuencia de las múltiples resoluciones judiciales que en consonancia con lo que nos ha dicho el tribunal de la unión europea ponen coto

nacionales señores en la política toca ser valiente y hacer lo correcto este es el momento en el que estamos ahora y en este caso

de que los acontecimientos nos fuercen por eso señorías solicitamos a esta cámara que se tome en consideración la tramitación de la reforma que pretende eliminar un artículo cincuenta y siete punto cinco ya hablaremos de las futuras modificaciones

externo pero no queremos que se espere dos años o tres podemos eliminar esa figura en apenas un mes no impediría los males causados lo sabemos

creemos que no merece la pena que siga en vigor

que se sientan estafados que tengan sus ahorros en peligro o se diluyan cuando los han necesitado y por el contrario sí merecen

que se arbitre en su caso por la vía abierta pero también la respuesta política que debemos desde esta cámara dar para que sepan que no se volverán a producir los abusos
que han provocado la incorrecta utilización de estos instrumentos financieros muchas gracias eskerrik asko sarasua

gracias presidenta buenos días a todos señor lehendakari el grupo socialistas vascos nos propone la supresión del artículo ocho de la ley uno barra dos mil de veintinueve de junio de modificación de la ley de cooperativas de euskadi

número cinco al artículo cincuenta y siete de la ley del año mil novecientos noventa y tres podemos repasar la historia y cómo hemos llegado al día de hoy cómo hemos llegado a este planteamiento del grupo

que nosotros apoyamos como ya lo hemos hecho por cierto en otras ocasiones porque no es la primera vez que

en esta cámara con fecha veintinueve de junio de dos mil el gobierno de ibarretxe modifica la ley de cooperativas de euskadi con el objetivo principal de que las cooperativas se financiaran a través de las aportaciones financieras

este producto financiero además de formar parte del capital social de la cooperativa podía garantizar el carácter de recurso propio en base a las normas internacionales de contabilidad siempre que no se otorgara un derecho de rescate anticipado a sus titulares como se dice en la justificación de la iniciativa

instrumento para capitalizar las cooperativas en fin qué son las aportaciones financieras subordinadas ciertamente a día de hoy todos sabemos ya qué son

producto financiero no son participación social sino títulos de deuda perpetua y subordinada

o por créditos ordinarios hemos debatido en bastantes ocasiones el asunto de las aportaciones

en este parlamento upyd fue el primer grupo que trajo este asunto a debate hemos sido coherentes con otras actuaciones en otros ámbitos ahí están la querella bankia o la querella de las preferentes presentadas por upyd se trata en definitiva de defender la justicia y la regeneración de la democracia frente a los abusos y la impunidad

básicamente para denunciar los hechos y para pedir el reembolso inmediato del cien por ciento del capital invertido a aquellos consumidores con un perfil conservador el reembolso inmediato del cien por ciento del capital invertido a aquellos consumidores sin experiencia inversora previa sin cultura financiera y sin formación suficiente aquella iniciativa debatida el día veintiocho de febrero

partido nacionalista vasco y por eh bildu quienes consiguieron aprobar una transaccional firmada entre ambos grupos que ni siquiera citaba a los responsables de este fraude

aquel pleno fue una decepción para muchos ciudadanos vascos víctimas de la comercialización fraudulenta de las aportaciones financieras subordinadas sin embargo a partir de unas declaraciones de la exdirectora de kontsumobide señora

de los hechos el asunto volvió a este parlamento en varias ocasiones a través de varias mociones de distintos grupos y distintas comparecencias

abocados a graves problemas económicos y a sufrir situaciones personales y familiares desoladoras se trata de solucionar sus problemas pero también se trata de que hechos parecidos no vuelvan a suceder este producto financiero es un producto a las preferentes ciertamente se trata de un producto financiero de alto riesgo de duración perpetua y cuya liquidez más bien escasa o nula depende del mercado

es que toda la información de la que ahora disponemos sobre las características de este producto financiero no la tuvieron los consumidores estafados estos padecieron ausencia de información o información parcialmente contada

manipulada se trata por tanto de un producto legal a día de hoy pero comercializado de manera fraudulenta colocado a personas con las que existía un alto grado de confianza y obviamente ahí está la estafa y ahí está el fraude la comercialización y efectivamente

en el que se puede producir esa estafa y esa comercialización y el propio producto cuyas características facilitan el engaño y el fraude el problema es que haya habido entidades financieras que nos hayan trasmitido a nosotros

únicamente para tratar de salvar sus responsabilidades el problema es que muchísimos de ellos miles la mayoría de ellos ahorradores nunca inversores fueron engañados y estafados no se les informó adecuadamente de que se encontraban ante un producto de alto riesgo con escasa o nula liquidez

según los testimonios con los que contamos fue iniciativa evidentemente de las entidades financieras que estos productos se colocaron inicialmente ni siquiera se conocían por lo que es impensable que se produjera una marea de solicitudes motu proprio por un producto que era desconocido

de que este producto les interesaba y les convenía recibiendo a continuación una información sesgada incompleta o manipulada una información

creo que hoy ya nadie duda de estos hechos en fin estamos hablando de miles de ciudadanos afectados ciudadanos que merecen una solución justa

de responsables que llevaron a cabo actuaciones muy poco honestas muy poco profesionales y muy engañosas durante todo este tiempo hemos venido denunciando la estafa el engaño masivo y el fraude es decir

y a exigir al gobierno vasco aunque no solo al gobierno vasco que haga todo lo que esté en su mano para atender a los ciudadanos estafados y que efectivamente

en el futuro hemos mostrado durante todo este tiempo distintos grupos nuestro más profundo rechazo a la realización de prácticas contractuales abusivas

desplegadas para realizarlas basadas en conseguir la confianza de los ciudadanos más vulnerables incluida la comercialización engañosa y fraudulenta de determinados productos financieros en nuestra opinión las entidades emisoras y las entidades bancarias colocadores deberían adoptar

el cien por ciento del capital invertido por un lado a aquellos afectados y afectadas con un perfil de riesgo conservador que así lo deseen

una información insuficiente tendenciosa incompleta o engañosa entendemos que sería lo más justo ahora el grupo socialistas vascos como en otras ocasiones nos ha planteado nos plantea nuevamente esta modificación legal que nosotros vamos a apoyar

de que los abusos que se han constatado en la emisión y comercialización de las mismas no se vuelvan a producir nunca más

esta iniciativa el gobierno vasco ha manifestado su criterio desfavorable aduciendo una serie de razones puestos en una balanza

por el grupo socialista se trata de que los abusos constatados no puedan volver a producirse el gobierno vasco viene a decirnos ahora que el problema no es el producto

el problema es el modo en que se comercializó pero también el producto y el contexto en el que la comercialización de este producto

el gobierno vasco destaca que la comercialización del mismo se produce bajo la supervisión de la comisión nacional del mercado de valores el mismo organismo

de las preferentes en calidad de cooperador necesario junto con el banco de españa

es el problema de vivir en un país donde se emiten preferentes y aportaciones financieras subordinadas sin otro objetivo que estafar

es el problema de vivir en un país donde los órganos de supervisión

y no funcionan y es el problema de vivir en un país donde la justicia depende de los partidos políticos y de sus intereses partidarios en esta situación y en este contexto lo mejor que podemos hacer es suprimir cuanto antes esta figura

la comercialización fraudulenta favorece y como hemos visto permite y por lo tanto en esta situación lo más razonable es modificar la ley y suprimir esta posibilidad suprimir la posibilidad de que existan las aportaciones financieras

en nuestra opinión el problema es el producto el problema es la comercialización del producto el problema son los órganos supervisores que no funcionan en españa y el problema es la legalidad vigente y en concreto esta ley todo ello ha hecho posible esta estafa todo ello todo este contexto es lo que ha posibilitado

ya digo el producto la forma de comercializar este producto los órganos supervisores que no funcionan en españa y la legalidad vigente

un contexto en el que se permite la comercialización fraudulenta de las aportaciones financieras subordinadas y por lo tanto apoyamos la modificación legal que se nos propone por eso votamos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley del grupo socialista

víctimas de futuras estafas y por esto digo votamos a favor de la toma en consideración gracias

buenos días señora presidenta señoras y señores parlamentarios lehendakari miembros del gobierno

desacertada por las formas y por el fondo cuando menos incompleta no negamos que la legislación de cooperativas se pueda reformar se pueda mejorar y que el asunto de la financiación externa de las cooperativas pueda estar regulado de una manera más eficiente

eso desde luego que no lo negamos pero señora sarasua si no existiese

cuatro barra mil novecientos noventa y tres de cooperativas de euskadi debiera de existir otra fórmula y ustedes no la proponen en su iniciativa ustedes solo pretenden suprimir un artículo en vigor sin alternativa legal lo cual

supone la máxima expresión de la inseguridad jurídica los efectos de la eliminación del apartado cinco

prosperara finalmente la proposición de ley formulada por su grupo además de cortar drásticamente las vías de captación de financiación con consideración de fondo propio por parte de las cooperativas supondría

fuera necesaria la reclasificación como pasivo exigible a las aportaciones financieras subordinadas ya contratadas o emitidas un impacto inasumible en los balances y en las ratios de las cooperativas

entendemos solo en el caso de eroski de fagor electrodomésticos y de mondragón inversiones

y un importante brutal deterioro tanto en los ratios de balance como en los financieros digo de aprobarse toda esta cuestión como ustedes lo plantean yo le quiero decir que amparar a los pequeños ahorradores no tiene nada que ver con generar inseguridad jurídica en empresas que generan empleo

lo que habrá que hacer será mejorar las garantías de comercialización no perjudicar a las cooperativas compartimos el criterio del gobierno vasco emitido con motivo de la toma en consideración

de lo que es la comercialización de las aportaciones financieras subordinadas se trata de un problema el sucedido con las aportaciones de eroski y fagor de consumo de productos financieros

además ha de considerarse que no solo existen las aportaciones de eroski y de fagor sino que han existido existen otras

precisamente esas empresas a la hora de aprobarse la iniciativa que usted plantea

en el punto ocho de su criterio ha dicho que es propósito

refundición de la normativa cooperativa vasca con introducción

en su redacción y que podría agregarse a la regulación actual alguna cláusula

supervisadas por las autoridades económicas competentes pues será para autorizar la emisión pues garantizaría esa cláusula pues la información suficiente por los

terceros no socios en relación con este tipo de producto financiero bueno pues ahí está ya veremos qué planteamiento hace el gobierno vasco

y bueno analizaremos yo creo que por ahí puede estar la clave de algunas de las preocupaciones que usted manifiesta

que moverse en el de modificar para mejorar

no para anular la financiación ajena a las cooperativas se trata del único instrumento y así está planteado el único instrumento

financiación de terceros a modo de recurso propio y eso está regulado de esa manera y ustedes desde luego no presentan ninguna alternativa a lo que es una necesidad que tienen las empresas de financiación ajena externa

de isla del país vasco la regulación no es exclusiva en esta cuestión del país vasco no se trata de un instrumento

cuatro barra mil novecientos noventa y tres el resto de las leyes autonómicas que regulan el régimen de las sociedades cooperativas así como la propia ley general de cooperativas de ámbito estatal prevén este tipo de figura

ocasionado problema ni en el ámbito estatal ni en el ámbito de comunidades autónomas

este tipo de planteamientos legales y normativos es decir el artículo cincuenta y siete de la ley de cooperativas de la comunidad de madrid el artículo cincuenta y tres de la ley de cooperativas de ámbito estatal

noventa y cuatro del principado de asturias el artículo ochenta y cuatro

de cantabria pues todos establecen este tipo de regulaciones y vuelvo a decir en comunidades donde ustedes han gobernado y en ámbitos donde ustedes

con este tipo de regulaciones en relación con la financiación

señora sarasua el sector no comparte no comparte lo manifestado por su señoría en cuanto a la inutilidad de la ley

artículo cincuenta y siete punto cinco el sector no lo comparte al contrario ya nos lo ha hecho llegar y a ustedes supongo que también nos han hecho llegar precisamente lo peligroso que sería

una medida como la que ustedes proponen una medida supresora pero sin ninguna alternativa es decir una medida de destrucción una medida que lo único que puede hacer es generar inseguridad jurídica esa no es la vía desde luego para resolver los problemas de los pequeños
y de los afectados por los problemas de comercialización de un producto financiero legal y autorizado muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

a la toma en consideración de la modificación de la ley de cooperativas mediante la cual se quiere modificar el artículo referente a la financiación de las mismas euskal herria bilduk

diezue no podéis engañar a la sociedad y poner a las cooperativas como las únicas causantes del fraude y ello sin quitar

por no haber realizado seguimiento de la venta del producto financiero el fraude y así lo ha dicho el ararteko ahora lo dice kontsumobide jueces mediante sus sentencias y también así lo han dicho cada uno de los agentes y representantes de asociaciones

lo han acometido las entidades financieras entidades financieras que deberían dar información y no la dieron entidades financieras que mintieron a los compradores

entidades emisoras que comercializaron ese producto y vendieron todo lo que pudieron y más entre la clase trabajadora y han arruinado a familias enteras

erantzule nagusiak ustedes saben que ni el banco santander ni el bbva quienes además son los máximos responsables

y colocadoras han venido a la comisión que les citó aun cuando les hemos dado esa oportunidad pero ustedes prefieren hacer ruido y no traer soluciones quieren una solución por qué no ponen el peso de la culpa en el sistema financiero euskal herria bildu lo hizo desde el inicio

con ninguna entidad financiera y eso nos hace libres para poderles cantar las cuarenta al sector más podrido de la economía al sector financiero sector responsable de suicidios de pobreza y de envilecer esta sociedad los dirigentes de esas grandes entidades financieras son los que deberían dar explicaciones ser juzgados y condenador por el delito de usura

y controlan el maltrecho estado español ahogándolo a través de la deuda

es que hemos de reconocer que la propuesta tiene sentido pero tiene sentido en el contexto adecuado es decir cuando las cooperativas las entidades emisoras

y los y las afectadas hayan llegado a un punto de acuerdo para resolver su situación

sino que les ponen posiblemente en un problema de balance que les genera una situación de quiebra

a los y las afectadas o pagar ese dinero a los bancos

en el problema que ustedes quieren generar si las cooperativas no conocen quiénes son sus financiadores es decir quiénes son los dueños de esas aportaciones subordinadas porque esos datos los tienen únicamente las entidades financieras

anulan los contratos entre las entidades financieras y los y las afectadas estaríamos una vez más solucionando un problema generado por la banca ya que en definitiva las cooperativas

favoreceríamos a los bancos aun siendo los culpables de este fraude social hori guztia kontuan izan duzue gaur aurkezten duzuen proposamena idazterako orduan

para que solucionasen los problemas en los balances que podrían sufrir al pasar de considerar ese dinero como fondos propios a otro escenario que quizás les llevase a la quiebra

por ello desde euskal herria bildu pedimos que todos los grupos cojamos el compromiso de volver a debatir sobre la propuesta

pero cuando el problema es social generado por la comercialización fraudulenta de las aportaciones subordinadas se haya encaminado hacia una solución

demos un tiempo prudencial para que los intermediarios y las vías judiciales vayan aclarando el terreno

una vez que eso esté hecho apoyaremos sin duda esa modificación e intentaremos consensuar con el resto de grupos y cooperativas las vías existentes para la financiación euskal herria bildu lo hará sin miedo ya que nunca apoyaremos el mantenimiento de esos subproductos financieros

y por supuesto seguiremos señalando a los bancos y cajas que engañaron y timaron a los pequeños ahorradores para conseguir un porcentaje de beneficio sobre el total de la venta

cualquier endurecimiento sobre la ley de productos financieros y por conseguir mayores controles sobre el sector de la banca privada

soy parlamentaria vasca del grupo socialista lo digo porque luego probablemente hablaremos también de madrid y del congreso el día seis de junio el grupo socialista

ya propuso la eliminación de este artículo y fue rechazada con los votos en contra del partido nacionalista de bildu y del partido popular

algunos grupos dicen que no firman con otros pero bueno esta es la realidad que tenemos y así nos va señores

que no se debe tapar un problema que existe con las aportaciones financieras coordinadas y

y por lo tanto considero que es un problema grave como he dicho en mi anterior

ustedes han justificado su voto en contra de esta toma de consideración porque dicen que se crearía una inseguridad jurídica a las cooperativas si se eliminase ese artículo cincuenta y siete punto cinco que concretamente en este caso me imagino que se refieren ustedes que no lo nombran a eroski y a fagor

que podrían tener problemas me imagino que se refiere

este tipo de productos que figuran en este momento en capital social a deuda y yo les quiero hacer igual una apreciación

las tres primeras emisiones de eroski que ascienden a trescientos sesenta millónes de euros ya figuran como deuda en los balances y no me lo invento lo saqué anoche y están aquí

de los trescientos millónes que figura como capital social eso por un lado por el otro lado en el caso de fagor lo mismo la emisión del dos mil cuatro

es la que queda la del dos mil seis la de ciento veinticinco millónes la que quedaría como capital social por otra parte dicen que el partido socialista no plantea alternativas

nosotros estamos planteando y precisamente eh bildu suscribió con su voto afirmativo un acuerdo el seis de junio nosotros ya planteamos alternativas una solución global sí señores

lo que se conoce como senior y tendríamos que estos productos también serían deuda

no se sostendría el mantener este artículo cincuenta y siete punto cinco

creo que todo eso es apreciable debatible y se puede llevar a cabo

es decir el capital de los vascos y de las vascas se ha invertido fuera eso también lo eluden

y por ejemplo en el caso de fagor yo que he estado mirando esa emisión del dos mil seis

miren ustedes dónde se invirtió y cuáles han sido sus resultados y qué problema está generando a fagor

insistir en los que hoy votan en contra de la toma en consideración de esta proposición pues bueno

de lo que dicen en madrid porque apelan ustedes al grupo socialista y a lo que nosotros décimos en otros parlamentos y lo que ustedes dicen en madrid se lo voy a leer pero así de forma breve le voy a decir lo que dice el señor azpiazu uriarte

me han precedido en el uso de la palabra porque sinceramente pensamos todos que la comercialización habla de las preferentes no habla en ningún momento de las subordinadas ha sido una auténtica estafa en el informe del defensor del pueblo dice claramente que es un producto de riesgo con lo que se puede ganar y perder dinero y que es a perpetuidad

cualquier entidad financiera en cualquier folleto todos los que iban a esa entidad no hubieran invertido nada

de los afectados de los estafados podríamos considerar que lo más razonable y lo más justo sería que todos al cien por ciento de los afectados recuperasen su dinero pareceríamos más serios y más razonables a pesar que en muchos casos se ha visto que los dirigentes

tampoco eran gente muy seria y muy razonable en este caso se refiere a los dirigentes de las entidades financieras y le voy a decir lo que dice el señor

no nos olvidemos de si uno ha sido responsable en una época o en otra y vayamos a resolver los problemas de las personas

que son personas concretas que exigen soluciones qué soluciones dan ustedes eskerrik asko

gracias presidenta lo que básicamente han dicho los portavoces que se oponen a la toma en consideración de esta proposición de ley es algo así como que esto no nos podemos permitir y yo creo que lo que no nos podemos permitir es lo que ya ha sido permitido y ha sido la estafa de

existe un producto que en nuestra opinión es un producto tóxico y que además ha sido comercializado

esto sí que es lo que no nos podemos permitir es decir que vuelvan a ocurrir estos hechos y por eso tiene todo el sentido efectivamente esta

eliminar un artículo y de esa forma eliminar las aportaciones financieras subordinadas que son las que nos han traído hasta aquí no solamente las aportaciones financieras subordinadas sino ese contexto político del que hablaba antes efectivamente si existieran órganos supervisores que funcionaran o responsables políticos que impidieran

quizás sí podrían existir pero en el contexto en el que vivimos es evidente en nuestra opinión que a día de hoy no nos podemos permitir que sigan existiendo estas aportaciones financieras subordinadas efectivamente las cooperativas no son las únicas responsables hay más

este producto y a partir de ahí todo lo demás está el comportamiento de las entidades financieras lo hemos denunciado en diversas ocasiones en este parlamento

no funcionan no controlan este tipo de productos por lo tanto si no hay órganos supervisores que funcionen evidentemente este tipo de productos no pueden existir tampoco

que dan la espalda a los ciudadanos afectados es decir el partido nacionalista vasco el partido popular y eh bildu eh bildu que

siempre que hablamos de las aportaciones financieras subordinadas y más concretamente siempre que hablamos de eroski y fagor y siempre que hablamos de las cooperativas emerge el perfil moderado de eh bildu con los ciudadanos según dicen pero a la hora de la verdad

los intereses de las cooperativas y determinados intereses y eso es lo que ustedes están defendiendo ustedes hacen demagogia ustedes hacen mucho ruido

es de todos los demás pero a la hora de la verdad qué van a votar ustedes van a votar el mantenimiento de una injusticia en contra de la propuesta planteada

el grupo socialista ahora ustedes reclaman tiempo prudencial tiempo prudencial pide eh bildu en el debate de hoy tiempo prudencial

de esta estafa y pide a los demás soluciones y cuáles son sus soluciones más allá de bajar aquí y hacer demagogia todas las semanas y echarnos la culpa al resto de lo que ocurre de la crisis económica en fin de las entidades financieras de lo que no hacen y de lo que hacen qué hacen ustedes en realidad

en contra de esta proposición de ley que trata de que una determinada injusticia no pueda volver a suceder ustedes presentaron la querella a bankia

ustedes presentaron la querella de las preferentes ustedes han sentado en el banquillo de los acusados a varios de los

ustedes no han hecho eso upyd lo ha hecho upyd lo ha hecho

upyd ha presentado la querella a bankia la querella de las preferentes y ha sentado en el banquillo

poderosos que existen en españa esto es lo que ha hecho upyd y es el partido político que ha traído este asunto al parlamento y que ustedes quieren evitar y ahora dicen tiempo prudencial y emerge nuevamente

moderado de eh bildu para defender determinados intereses otra vez defendiendo determinados intereses en contra

afectados por esta estafa y este fraude otra vez como siempre eh bildu a favor de los poderosos gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta también hay planteamientos apocalípticos los planteamientos apocalípticos planteados por el señor lópez de munain y los planteamiento apocalípticos del señor maneiro uno con el tema

y el otro con la obsesión por las entidades supervisoras y con el tema del producto

los hechos que todos conocemos no es una cuestión de supresión de ese artículo no es una cuestión que lleve a generar problemas ahora

a miles de trabajadores de las cooperativas vascas no esa no es la cuestión la cuestión tiene que ser otra y estábamos hablando a través de la iniciativa que nos ha planteado la señora sarasua de que

y lo decíamos antes haber buscado una alternativa a la supresión que generaba inseguridad jurídica y que generaría además problemas a miles

de empresas que se tienen que financiar de alguna manera entendemos que es así

entendiendo además y diciendo que hay que mejorar la comercialización hay que supervisar hay que establecer garantías hay que establecer controles y además instar una vez más

para superar estos problemas en que la comercialización de las aportaciones financieras subordinadas

debates y planteamientos porque nosotros queremos apoyar a las cooperativas nosotros sí queremos apoyar las cooperativas nosotros somos el sector a través de sus representantes nos ha pedido nos ha solicitado que no sigamos el camino que marca este planteamiento esta iniciativa porque es un camino malo para las cooperativas y nosotros no queremos que haya caminos malos para

además yo me quedo con los planteamientos que sobre las cooperativas hace el reciente informe del parlamento europeo

de las cooperativas a la salida de la crisis el parlamento europeo se pronuncia firmemente a favor de las cooperativas para salir de la crisis el informe revela como las cooperativas además de mantener y crear empleo han salvado cientos de empresas en crisis o sin sucesor en los últimos años destaca también

en europa del sector de las energías renovables por ejemplo y en otros sectores en europa hay ciento sesenta mil cooperativas

que proporcionan empleo a cinco coma cuatro millónes de personas y

y datos muy importantes hay muchos más elementos importantes interesantes en ese informe sobre la contribución de las cooperativas a la salida de la crisis nosotros

en un espacio geográfico en una tierra donde las cooperativas tienen

empleo de crecimiento económico nosotros nos queremos quedar ahí y nosotros no queremos mezclar debates efectivamente si hay cosas que mejorar y que regular mejor

sacar la guadaña y poner en la inseguridad jurídica a determinadas cooperativas en este país yo creo que no es un planteamiento importante en este momento hay una hoja de ruta en la unión europea así lo ha manifestado también el comisario

y el tema del acceso a la financiación de la eliminación de trabas legislativas de servicios de apoyo de promoción y visibilidad de mejora de competitividad e internacionalización

importantes a los que hay que dar salidas y a los que hay que favorecer vamos a ver ese planteamiento en positivo vamos a ver que el planteamiento en positivo no es

a las cooperativas de una forma de financiación que puede ser mejorable y que la estudiaremos si hay alguna alternativa que se plantee pero la supresión por la supresión hoy es problemas
para miles de trabajadores también muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

yo a upyd no le culpo de absolutamente nada porque ustedes no pintan absolutamente nada con lo cual

decirle que aquí el que realiza demagogia y una semana tras otra semana nos trae los principios del movimiento es usted

una y otra vez a realizar demagogia y debate barato piden soluciones las soluciones desde euskal herria bildu las tenemos clarísimas y lo hemos dicho una y otra vez

del capital debe ser devuelto a todos los inversores quiénes deben devolver ese cien por ciento las entidades financieras comercializadoras por qué porque son estas entidades financieras comercializadoras

los datos de quienes son sus inversores no las cooperativas quiénes realizaron la comercialización y el fraude las entidades financieras es fácil pero es fácil para los que hemos ido a todas las comisiones y hemos escuchado a todos los afectados los que no hemos estado en todas

luego problemas para entender todo el problema quiénes están defraudando los bancos los bancos han defraudado así lo han dicho los jueces los jueces no han pedido que

invertido por los y las afectadas vaya directamente pagado por las cooperativas sino que han dicho que ese contrato queda anulado entre la entidad comercializadora es decir las cajas y los bancos y el cliente persona estafada

ustedes no están generando ningún tipo de arreglo no dan no quieren dar ninguna solución

y señalar a las cooperativas vascas y si queremos hablar de la reforma de la ley de cooperativas hablemos y evidentemente euskal herria bildu estará a favor

los productos financieros a través de los cuales se están

sobre todo pedimos una cosa que si no hay principio de acuerdo para la solución del problema actual porque parece que todavía no lo hay entre las cooperativas las emisoras y las personas afectadas hoy por hoy lo que estamos generando es otro debate sin haber cerrado el anterior

y así lo escuchamos todos en aquella comisión y todas podía ser en el corto plazo

tendremos que esperar sobre todo lo que no podemos hacer ahora es generar otro debate con toda la irresponsabilidad que ustedes

y ustedes lo que hacen es una modificación de ley sin contar con los afectados por esa modificación de ley y luego exigiendo un compromiso al resto

eso es demagogia eso sí es demagogia porque encima están engañando a la sociedad

de la nueva ley de cooperativas euskal herria bildu quiere tratar la ley de cooperativas evidentemente y también queremos hablar del trato fiscal que se recibe cuando algunas de ellas pueden funcionar como

queremos hablar también si es justo o no la diferencia entre la situación laboral de los socios y los no socios también fuera de estas fronteras

de esos países que son empobrecidos también queremos hablar de eso queremos hablar del modelo de cooperativas que sería bueno para euskal herria

en su conjunto cuando desde el gobierno se traiga esa modificación o cuando si no se trae cuando el resto de los grupos una vez encaminados el tema de eroski y fagor podamos hablar de esto tranquilamente luego señora sarasua usted me decía

en este caso las cooperativas las inversiones que han realizado eran fuera euskal herria bildu no ha ido nunca en un viaje con los empresarios vascos a colonizar otros países poniéndose un casco amarillo tampoco

eso lo tiene que buscar usted en la bancada de delante y en este lado pero no allí

y se vanaglorian ustedes también de cuando se realizan esos viajes y como

del estado español ustedes van a captar capital extranjero

en contra banatu zaizuen dokumentazioa

impulsamos a través de esta iniciativa es un instrumento importante para

pero es evidente que forma parte de una política integral

y tiene que desarrollarse basada en los acuerdos que en el pasado hemos ido alcanzando especialmente en la pasada legislatura con el gobierno socialista porque ahí están la ponencia de víctimas del terrorismo y sus resoluciones los actos

el día de la memoria el mapa de la memoria la ley de víctimas del terrorismo

los decretos de apoyo a las víctimas del terrorismo y a sus asociaciones

los decretos de reconocimiento y reparación a otras víctimas el memorial de víctimas del terrorismo que por cierto espero que el gobierno de españa en colaboración con el gobierno vasco sigan impulsando para que sea una realidad lo antes posible y por supuesto también el acuerdo plenario de marzo donde acordábamos el suelo ético y democrático básico para construir el futuro por tanto

aún siendo importante es un instrumento más es un instrumento que forma parte de un todo que desde luego esperamos

porque esta es la mejor forma de tener garantía de éxito porque son complementarias entre sí y permiten abordar la tarea que tenemos

convivencia de consolidar la memoria y la convivencia de una forma ordenada

y convivencia de una forma amplia inclusiva pero sin equiparaciones si se tiene en cuenta otros instrumentos que también se tienen que poner en marcha y es evidente que

porque nos queda mucho todavía por hacer porque desgraciadamente

memoria verdad y justicia que por lo tanto no se puede rescribir la historia queda mucho por hacer porque es evidente que tenemos que recuperar

a la violencia que tenemos que ser capaces de construir el futuro

que tenemos que hacerlo asumiendo todos principios éticos y democráticos básicos y desgraciadamente si tenemos en cuenta algunas cosas que hemos conocido en los últimos tiempos demuestran que tenemos mucho que hacer porque simplemente leyendo el comunicado

de manifiesto que queda muchísimo por hacer cuando dicen que consideran justa y legítima la llamada lucha armada o que

que se sienta en estos escaños que dice que tenemos que hacer lo posible para

la violencia las actividades terroristas hubieran tenido tienen o tendrán justificación en el futuro

del conflicto en definitiva tenemos una tarea muy importante y tenemos que construir ese futuro juntos pero haciéndolo sobre una historia real

de nuestro pasado haciendo una autocrítica de lo que cada uno hizo en el pasado

haciéndolo sobre unas reglas básicas de respeto a la legalidad a las reglas de juego democráticas que nos hemos dado a la pluralidad y a los elementos básicos de cualquier convivencia

hace algún tiempo en esta tribuna que la concordia no es olvido

el futuro que es necesario construir ese futuro pero

destacó que hay que pasar página pero en ningún caso hacerlo desde el olvido por eso el instituto de la memoria puede y debe impulsar acciones

no solo a la memoria de recuerdo homenaje atención a las víctimas gestionar esa memoria inclusiva a la que hacía referencia sin equiparaciones

presentado tenemos que trabajar para no rescribir la historia y que desde luego en ningún caso se trabaje

también dice que tenemos que hacer una política de memoria y convivencia que se ha de basar en el reconocimiento de la injusticia de la violencia

justicia y reparación por tanto estamos convencidos los socialistas que este instrumento el instituto de la memoria y la convivencia

igualdad pluralismo de la sociedad vasca permitirá que recuperemos para la convivencia democrática a esa gente como decía que estaba anclada

y también para abordar otras violencias de vulneración de derechos humanos que no deben quedar en el olvido que hay que abordarlas sin cortapisas sin ninguna clase

sigue escudándose en las víctimas del franquismo para no abordar las víctimas o las políticas de víctimas del terrorismo o al revés las que

del franquismo por lo tanto trabajar en memoria y convivencia es algo muy importante este es un buen instrumento y espero que la propuesta que trasladamos hoy cuente con el apoyo mayoritario de esta cámara en el convencimiento de que será un buen instrumento para trabajar por todo esto que he dicho muchas gracias

zuzenean erantzuten dio oroimena eta bizikidetzaren institutuak la memoria no es una obligación es un derecho ciudadano

de nuestra historia reciente hechos que supusieron una violación de derechos humanos sostenida

en nuestro caso y en cien años primero el episodio de la guerra civil segundo la etapa de la dictadura y más recientemente el tiempo de eta y de la violencia de motivación política

impulsamos la creación del instituto de la memoria y la convivencia la misión principal de un instituto de la memoria se orienta a rescatar destacar conmemorar y transmitir los valores y esfuerzos democráticos que en medio de graves episodios violentos pugnaron por defender la dignidad

los recuerdos de estas luchas constituyen un patrimonio democrático que debe ser conservado

y plural entre memorias solo tiene un límite debe poner a salvo unos mínimos democráticos no se puede utilizar para excluir

tampoco para rescribir una historia de legitimación de ninguna forma de terrorismo violencia o conculcación de derechos humanos el instituto será pues un organismo autónomo de derecho público que se dedique a la coordinación de las políticas públicas de memoria y convivencia

será la referencia de la red de centros espacios o eventos de memoria sus funciones más concretas se centrarán en promover actividades de conmemoración conservación investigación formación participación difusión integración consulta y divulgación todo ello buscando la interacción con los agentes institucionales

denunciando y reconociendo a todas las víctimas a todas las violaciones de derechos humanos a todos los sufrimientos injustos esa es la vocación de este instituto

no pretendemos contraponer sufrimientos tampoco contraponer iniciativas diferentes que guarden la memoria de las víctimas

y todas ellas deben servir para construir el futuro pero pretendemos hacerlo sin olvidar a nadie a todos aquellos que han sufrido injustamente violaciones de sus derechos humanos y lo hacemos buscando la coordinación de las políticas públicas en esta materia

contra otros espacios o lugares de memoria en euskadi afortunadamente aquí no comenzamos ahora a construir la memoria es más somos probablemente un ejemplo en el mundo

cuando la violencia estaba aún todavía muy presente no pretendemos por tanto contraponerlo con nada no nace contra nada nace a favor de la construcción de la convivencia

existen muchos se prevén más y a todos ellos pretendemos

ese es uno de sus objetivos principales este instituto no equipara violencias no justifica conflictos al contrario establece un principio básico lo injusto de la violencia sufrida en euskadi lo injusto de esa violencia y lo indefendible de sus planteamiento por lo tanto les pido a todos ustedes

que miremos hacía delante que nos seamos cicateros a la hora de buscar los orígenes o las intenciones de quienes la hemos presentado

y ese es el llamamiento que hacemos a todos los grupos de la cámara sumemos juntos para construir

tenemos un reto importante y no podemos defraudar a los ciudadanos no busquemos lo que no existe en el texto de la proposición de ley y mucho menos en las intenciones

sobre violencia sobre vulneraciones de derechos humanos en este país no solo mira al pasado la memoria

se proyecta lamentablemente al presente y hacía el futuro la inexplicable e injustificable operación policial contra herrira esta misma semana la agresión policial a una senadora el próximo juicio

nos indica que lejos de quedar en el pasado el relato de vulneraciones violencias y agravios el censo final del sufrimiento en este país tiene todavía

únicamente en formas gramaticales pretéritas con la que enfrentamos nuestras aportaciones y nuestra crítica a la proposición de ley presentada por el pnv

una mención previa a las formas en que se nos presenta esta proposición nuevamente se traen trabajos realizados en la anterior legislatura sin dar ningún margen

con las fuerzas ahora presentes serán los trabajos de esta legislatura los que nos ayuden a desbrozar el camino hacía la verdad y la justicia verdadero sustrato de la memoria

o conculcación de derechos humanos ados

la lectura con memoria de los hechos acontecimientos pasados cuestión desde la que apuntaremos nuestras enmiendas en el debate legislativo

a los que se les haya aplicado una reparación en justicia si falla una de las patas verdad o justicia el diagnóstico memorialista fallará

parciales porque serán hechos no suficientemente desvelados no adecuadamente expuestos o porque no recibieron una reparación y rehabilitación en justicia y la parcialidad en la memoria nos perseguirá recordándonos permanentemente el deber

el relato será lo que estos hechos nos cuenten en toda su extensión y en sus términos justos por eso nos revolvemos inmediatamente al ver que la objetividad aparece retorcida en la propia exposición de motivos de la ley proposamenaren zioen azalpenean bi dira azken berrogeita hamar urteetako

desagertzen da errugabetzen da galena grupos antiterroristas de liberación ere

atxiloketa arbitrarioak kontzeptuak sartzea ahazten denean con un instrumento como el instituto creemos

de los cuales son titulares todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos reconocimiento reparación rehabilitación garantías de no repetición

que imponen las reglas internacionales ante la vulneración de derechos humanos y es que en este texto

aparecen en el paisaje pero no son el eje del instituto se mencionan continuamente pero como el decorado de esta propuesta de ley ya que son

de la fachada principal del propio nombre del instituto se arranca del título del instituto la mención a los derechos humanos

en su versión pretérita en la tragedia de lo que fue su vulneración deben mantenerse en forma de supervisión y monitoreo constante en el caso de que

y deben mantenerse para sentar las bases para establecer las garantías de que en el futuro nunca más se van a repetir jamás otra vez

trabajaremos para que esta visión de centralidad de los derechos humanos no se pierda en la retórica amaitzeko elkarbizitza ere

gracias presidenta nosotros podríamos estar de acuerdo con la creación de un instituto

para euskadi pero no estamos de acuerdo con este instituto con las características y el contenido de este instituto

contundentemente esta iniciativa puesto que efectivamente se tomará en consideración presentaremos todas las enmiendas parciales que sean necesarias para convertir este instituto llamado de la memoria que ustedes crean en un instituto que haga realmente memoria de lo que ha ocurrido en euskadi en los últimos treinta años y se centre en deslegitimizar ética política y socialmente

que creo que es la asignatura pendiente en euskadi y lo fundamental que debemos hacer es un problema vivo a día de hoy podemos echar la vista atrás acaso unos pocos días y vemos qué es lo que ha ocurrido con la organización pro etarra herrira hay ciudadanos que están dispuestos a exaltar el terrorismo de eta y por lo tanto creo que esta debe ser la mayor preocupación de los demócratas

deslegitimar esas ideas que todavía hay una parte de la sociedad vasca minoritaria pero que siguen existiendo y que están dispuestos todavía a seguir

se llame herrira se llame herri batasuna o se llame eh bildu es decir hay todavía organizaciones pro etarras vivas

en esta cámara no hay partidos políticos que defiendan el franquismo

ninguno de los demócratas defendemos las torturas ninguno defiende la dictadura

las guerras carlistas que por cierto en esta proposición de ley no se citan u otras dictaduras anteriores

pero sí tenemos el problema de que a día de hoy incluso en esta propia cámara hay un partido político

que sigue sin condenar a eta y sin embargo está aquí presente ese es un problema vivo y por lo tanto creo que

centrarnos en ello ya digo presentaremos todas las enmiendas que sean posibles pero es ciertamente complicado que a través de las enmiendas parciales podamos corregir un texto que es ciertamente enrevesado y en muchos de sus apartados incluso dificultoso de leer

de la exposición de motivos de esta proposición de ley a personas que no son de upyd a ciudadanos normales y corrientes y no han entendido absolutamente

en fin no les van a dar a ustedes el premio a la escritura esto de su objetivo primero es canalizar promover y dar expresión a un diálogo ciudadano y creativo

su objetivo último es contribuir a la construcción dinámica y productiva de un ágora una plaza pública un encuentro social de valores para conseguir

o cuando se dice el auténtico cambio cultural se basa en el reconocimiento de este patrimonio memorial

su valoración positiva en cuanto constituye la memoria democrática la memoria de la responsabilidad y la instituye en un derecho civil que fundamenta una política pública y yo creo que tenemos margen para hablar de manera

y señalar cuáles son los problemas que tenemos a día de hoy en euskadi y todos sabemos cuál es el problema fundamental que existe a día de hoy en euskadi el problema fundamental es eta y que hay organizaciones

las ideas totalitarias de eta este es el problema fundamental que tiene euskadi por otro lado en fin ningún partido político que ha firmado esta iniciativa se ha puesto en contacto con nosotros en todo este tiempo tampoco en la pasada legislatura

para intercambiar opiniones o preguntarnos sobre lo que nosotros considerásemos no ha habido ese diálogo

mil novecientos treinta y seis la primera pregunta que se nos ocurre

por qué no se han ido hasta las guerras carlistas o mucho más allá no se condenan todas las violencias no condenan otras dictaduras habidas en otros siglos o las guerras carlistas o víctimas habidas a lo largo de toda la historia nosotros los demócratas denunciamos tantas veces como sea necesario

la dictadura franquista las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y los crímenes cometidos durante cuarenta años de dictadura

y denunciamos todas las vulneraciones de derechos humanos habidas incluso las habidas a lo largo de toda la historia las condenamos sin embargo hay un partido político a día de hoy en euskadi

la violencia que a día de hoy sigue viva lo que no admitimos es que pretendan diluir el terrorismo de eta en un maremagnum o que diluyan

aunque no lo pretendan porque efectivamente sé que hay grupos que no lo pretenden pero que finalmente se diluye el terrorismo de eta

en nuestra opinión sí en nuestra opinión se diluye porque

mezclar las cosas lleva a la confusión más cuando algunos episodios son presentes

otra vez por lo tanto la teoría del conflicto político que aflora en esta proposición de ley aunque efectivamente algunos de ustedes no lo pretendan en nuestra opinión

cada uno de los cuales tuvo sus propias víctimas no estamos

cabe recordar que quien ha roto la convivencia durante estos treinta y cinco años de democracia ha sido eta y los representantes políticos que la han sustentado apoyado y aplaudido aquí presentes insisto todos condenamos el alzamiento militar de franco la represión franquista el contraterrorismo ilícito o las torturas cuando se hayan podido producir sin embargo hay quienes siguen sin condenar a eta este es el objetivo fundamental

y que hay una parte de la sociedad vasca que sigue dispuesta a legitimar esas acciones criminales de eta lo procedente es poner todos los esfuerzos en deslegitimar las ideas los fines y los medios de eta hay quien pretende a día de hoy legitimar a eta

y que tiene a día de hoy es eta es el terrorismo de eta

lo que deberíamos hacer sería dedicarnos a defender el estado de derecho que es la mejor forma de defender la convivencia y hacer mucha pedagogía política y mucha pedagogía democrática empezando por la educación y también en este parlamento explicar que las leyes deben cumplirse y que las leyes pueden cambiarse pero a través de los procedimientos legales establecidos explicar que no todas las ideas son democráticas y que no

deben poder ser realizables puesto que los hay que son un peligro para la propia convivencia y para la democracia explicar que todas las ideas democráticas

y que deben defenderse con la voz y con la palabra

a nuestros jóvenes estos valores de convivencia y de respeto a los derechos humanos y hay que decirles también a nuestros jóvenes y a nosotros mismos que en euskadi existen

y que estos se resuelven o no a través de los procedimientos establecidos que españa es un país democrático con una democracia mejorable obviamente pero un país democrático e insistir en la educación en valores en hacer justicia

y de la sociedad no se puede pretender falsear la historia vamos a defender que no haya ni un solo gramo de impunidad

como si fuera un problema de nuestros días insisto no hay partidos políticos a día de hoy franquistas pero sí hay partidos políticos

decía el señor ares que este instituto

y de la convivencia nosotros no lo vemos tal como está planteado y se lo digo

pensamos que está mal planteado y que se mezclan

mezclarse y que no es el instrumento que euskadi necesita a día de hoy para solventar el mayor problema que tiene que es la existencia de eta y que hay una parte de la sociedad que sigue legitimando

realmente el instrumento apropiado para seguir ese camino además de todo lo que he dicho antes la educación en valores

es defender el estado de derecho como forma de defender la convivencia

no ha partir del año treinta y seis sino a lo largo de toda la historia

eso se hace defendiendo la voz y la palabra defendiendo el estado de derecho creo que a eso deberíamos dedicarnos y por eso creo que este

no va en la dirección correcta y por eso votaremos en contra gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

egun on guztioi buenos días a todos

hoy va a aprobarse latoma en consideración de esta proposición de ley y

desde ahora que nuestro deseo va a ser el de votar afirmativamente votar positivamente respaldar el texto que salga de la ponencia que se constituya a tal efecto pero hoy

que lamentablemente lo que viene a este parlamento reconocemos y así se lo digo que no nos convence y quiero decirles que es una auténtica pena que se hagan así las cosasen euskadi

y que nos parece absolutamente lamentable esta nueva torpeza por parte de los proponentes del texto que hoy se somete a consideración y lo voy a justificar en primer lugar entendemos que es profundamente inoportuno que es un error plantearlo

ahora y en estos términos una cuestión son las buenas voluntades aquí expresadas las cuales no pongo en duda

y otra cuestión muy diferente son las circunstancias concretar por las que atraviesa euskadi

demostración de esto que les estoy diciendo en la intervención del portavoz de eh bildu el señor

y de cómo van a aprovechar algunos sus pretendidas buenas voluntades la realidad en la que nos movemos es que la banda terrorista eta hoy derrotada

y quienes insisten permanentemente en mirar para otro lado cuando deslegitimar la trayectoria de la banda terrorista se trata y tampoco podemos obviar el comunicado de la banda terrorista

pasada lo que hacen es justificar su comportamiento

y mezclarlo todo con un presunto conflicto y con una historia del franquismo y de la guerra civil y esto es una evidencia tan real

que debería de justificar una mayor habilidad por nuestra parte

que ese discurso se imponga que el relato de los liberticidas se imponga y que lo haga poco a poco

e inoportunamente este proyecto no es tampoco lo suficientemente claro y concreto para que ese temor de manipulación por parte de los

quede arrumbado nosotros no estamos de acuerdo con el proyecto que hoy viene a la cámara primero como les digo por inoportuno en segundo lugar por la confusión que genera e indefinición también del contenido del mismo

ese alambicado lenguaje de la política vasca se reproduce esa generalización tan extrema se pierde en la nada esa mezcla de conceptos de responsabilidades de circunstancias que al final no son útiles para lo que los proponentes pretenden conseguir y estoy absolutamente convencido insisto para que nada le quepa ninguna duda

la defensa genérica de los derechos humanos que se sostiene aquí es la misma que se defiende en el plan de paz y convivencia presentado por el lehendakari el pasado once de junio una defensa genérica

que han llevado precisamente a su vulneración igualando todas las violaciones de derechos humanos se iguala también a todas las víctimas y frente a la igualación de todas las víctimas quedan igualados

fueran producidas como les digo no esperamos ninguna mala intención de los grupos proponentes pero la realidad es que

para enmarañar aún más la realidad y justificar lo injustificable trasladando la culpa a no sé qué ancestros que tuvimos en otros tiempos de las barbaridades que hoy en el mundo de hoy ellos mismos han protagonizado cuando no jaleado y justificado políticamente

hoy el texto que hoy van a apoyar tal y como está redactado y el debate actual que se está sucediendo en las calles del país vasco lamentablemente puede servir para que eta y quienes les jalean busquen justificaciones

de hoy mezclar las cosas los conceptos las circunstancias buscar

a la confusión a la manipulación y a la justificación de la violencia que es lo que está buscando eta y su entorno con esto mismo que estamos tratando hoy aquí

ni la convivencia todos sabemos perfectamente quién no ha respetado la democracia

y lo mismo que hoy afortunadamente no hay ninguna formación política que justifica el totalitarismo de la dictadura franquista

de la dictadura de eta y sus atentados todos sabemos quiénes han querido pero no han podido destruir nuestra sociedad

y aniquilar físicamente a sus hermanos y a sus vecinos

y su mundo no hay justificación

que expliquen ni justifiquen lo que ha sucedido aquí en los últimos años justamente durante los mismos años en el que este parlamento en el que la democracia a través de este parlamento se expresaba en euskadi pero como les decía además de generar confusión

además es confuso en su función los mismos proponentes de esta iniciativa han aprobado

que tiene tres fundamentos la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo la difusión de los valores democráticos y la educación en valores éticos y democráticos este instituto que hoy plantean viene a vaciar el contenido del centro de la memoria

el término memoria en más de cuarenta ocasiones y abarca desde la guerra civil a nuestros tiempos

y se proponen una serie de funciones que resumidas van de la conmemoración y la investigación a la formación y la consulta pero volvamos a la realidad

que ya existe y que busca además conservar exponer difundir investigar y educar al visitante

me dirán ustedes cuáles son las diferencias notables con esto que están planteándonos hoy

pero también contamos con otro instrumento con otro organismo

que pretende y abro comillas contribuir con aportaciones generadas o respaldadas por una reflexión científica al logro

a escala mundial esto a nuestro juicio además de otras consideraciones de orden político se llama triplicar recursos

en medio a ustedes no se les escapa de una crisis económica sin precedentes y cuando los gobiernos precisamente están elaborando planes para racionalizar la administración

difícil racionalización es esta cuando se triplican los objetivos a través de tres organismos diferentes

y recursos económicos y una disposición adicional segunda para gastos y dietas de sus futuros integrantes claro los cuales a saber serían

un director un director adjunto y un consejo de dirección formado por nada menos que veintisiete

y se cuente pero señorías la realidad a parte de todo esto es que en mil novecientos setenta y ocho es cuando de verdad

es en mil novecientos setenta y ocho cuando la sociedad española en su conjunto y la vasca en concreto también decidió enterrar

y es cuando decidimos convivir y vivir en democracia

menos aquí menos aquí en todos los lugares de españa menos aquí porque la sociedad española

en el año mil novecientos setenta y ocho a su negro pasado pero los vascos no hemos podido hacerlo a los vascos se nos ha impedido

en igualdad de condiciones que el resto de los españoles porque todavía aún hoy

en dos mil trece aún hoy hay quienes buscan justificaciones

todavía hay muchos vascos que siguen usando el doble lenguaje que sirve lo mismo para un roto que para un descosido todavía hay muchos vascos apologistas de la lucha de no se sabe qué lucha armada de no se sabe contra qué ni contra quién pero una lucha armada

que ha sido en cualquier caso contra los vascos y contra la democracia y por lo tanto somos nosotros los que tenemos el problema

los vascos y más en concreto somos nosotros los políticos vascos los que hemos sido incapaces y con torpezas como la de hoy los que demostramos que somos incapaces

para poder resolver el problema que padecemos en primera persona los vascos no son nuestros padres ni son nuestros abuelos

los que tienen la responsabilidad somos nosotros ahora los políticos de ahora tenemos la oportunidad de construir un relato

ahora y somos incapaces de hacerlo nos perdemos en debates estériles

somos manifiestamente incapaces de acordar lo mínimo

sobre lo que eta ha supuesto para los vascos y somos incapaces de acordar su deslegitimación y la realidad

vamos a ser nosotros lo que esta generación política en esta casa sea capaz de hacer y la realidad es que no hemos conseguido erradicar esa españa negra de la que les hablaba porque sigue aquí representada

esa españa de la intolerancia y del odio

responsabilidad también nuestra no somos capaces de hacerlo pero por elevación debatimos sobre lo que padeció españa hace setenta años

ahora y finalizando señoría señora presidenta

si la ponencia es clara y rectifica las deficiencias que les acabo de enumerar nosotros respaldaremos las conclusiones de esa ponencia

vamos a participar en los debates y vamos a intentar corregir lo que a nuestro juicio está mal este error si esa ponencia traza una raya

que han machacado a euskadi nosotros estaremos en el acuerdo pero si no traza esa raya y esa es nuestra responsabilidad insisto como políticos además de ser una inmensa equivocación será una nueva frustración para esta tierra como les decía la libertad con todos sus defectos empezó en el año mil novecientos setenta y ocho y solo unos muy concretos

esos que se llaman eta luego se llamaron herri batasuna y ahora se llaman bildu no quisieron sumarse a la democracia y la libertad e impidieron que los demás

y ni tan siquiera eso hemos sido capaces de acordar poner negro sobre blanco en este parlamento ese es

pero es también nuestra vergüenza muchas gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta señor semper yo prefiero quedarme con

de presentar enmiendas y de mejorar el texto para apoyarlo cuando este salga de la ponencia tenga la seguridad que analizaremos en profundidad sus sugerencias

el máximo diálogo y que el proyecto cuente con el máximo respaldo en este parlamento en todo caso

el texto en ningún caso recoge nada que avale o justifique o

la promoción defensa de valores éticos y democráticos y la defensa de todos los derechos humanos y trabajar para evitar su vulneración otra cosa es que como he explicado este

por cierto una pieza más de la que es muy importante

en absoluto lo vacía todo lo contrario si su gobierno hubiera estado ágil ese instituto tenía que haberse creado ya estaría en funcionamiento

tener instrumentos complementarios que no mezclen estaríamos en mejores condiciones porque es verdad

el memorial de víctimas del terrorismo tiene un objetivo fundamental que es atender reivindicar dar respuesta a las víctimas del terrorismo y también

si no se sigue adelante con el memorial lo reivindiquemos desde aquí usted haga las gestiones oportunas para que sea una realidad lo antes posible el instituto

defender valores éticos y democráticos de pluralidad tolerancia respeto a las reglas del juego y a la legalidad es un instrumento más

espero que también usted pueda si lo desea presentar enmiendas pero quería dedicar esta parte de mi intervención a comentar a dar mi opinión en relación con

tiene como objetivo desarrollar políticas públicas para la defensa de todos los derechos humanos para defender valores éticos y democráticos de convivencia paz

cuando ustedes nuevamente se han incorporado a este parlamento y no es así

en este parlamento llevamos mucho tiempo dialogando buscando acuerdos construyendo consensos para trabajar en la política que tenemos que desarrollar en la lucha contra el terrorismo

y la convivencia y ustedes tendrán toda la oportunidad del mundo como otros de presentar sus enmiendas pero mire

ciudadanos vayan sabiendo cuál es la posición de cada uno los socialistas vascos

todas las vulneraciones de derechos humanos repudiamos todas las vulneraciones de derechos humanos trabajamos para que no haya vulneración de derechos humanos

que rechaza repudia condena la vulneración sistemática de derechos humanos que ha producido eta tenga el coraje y la valentía de decir aquí en nombre de su grupo que ustedes hacen autocrítica de su pasado por el apoyo y justificación que le han dado a la violencia terrorista pídale a su portavoz que rectifique

que rectifique porque eta no tuvo no tiene y nunca tendrá razón de ser como no tuvo no tiene y nunca tendrá razón de ser el terrorismo

cuando ustedes hagan todo esto seguramente es más fácil entendernos y lo que es mucho más importante cuando ustedes hagan todo esto que tienen que hacer será cuando de verdad podamos entendernos trabajar juntos para construir el futuro porque nosotros queremos construir el futuro junto con ustedes pero sobre unas bases sólidas éticas y democráticas no sobre amnesias sobre olvido

la historia de la memoria el reconocimiento y la reparación de los derechos humanos no empieza con la ilegalización de sortu ni con la constitución de bildu de

por lo tanto traemos propuestas de anteriores legislaturas porque afortunadamente lo decía en mi primera intervención

capaces y hemos dado ejemplo de encarar procesos de reparación reconocimiento a las víctimas de construcción de la memoria cuando todavía la violencia estaba en plenitud respecto a

del título de la ley eso responde como bien sabe a la nueva configuración

en una secretaría general para la paz y convivencia que incluye también a los derechos humanos y que

respondía mejor a esta nueva configuración y no a nada más

la proposición recoge a todas las víctimas de todas las violencias de derechos humanos

a pesar de que haya leído usted un párrafo en el que se cita exclusivamente a eta existen varias referencias expresas tanto en los antecedentes jurídicos como en la exposición de motivos tanto a la ley cuatro barra dos mil ocho por ejemplo de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo

al batallón vasco español a la triple a se recoge también en el decreto diecisiete barra dos mil doce declaración y reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos por lo tanto sí hay referencias sí es una exposición de motivos sí es una proposición de ley

no contrapone sino que pretende reconocer reparar construir la memoria con el respeto a todas las víctimas

de violaciones de derechos humanos por qué a partir de mil novecientos treinta y seis bueno

creemos que es la historia de las graves violaciones de derechos humanos en este país en este siglo

esta proposición de la misma manera señor maneiro que las leyes de víctimas del terrorismo pues empiezan en mil novecientos sesenta leyes que usted la del congreso no la apoyó por ejemplo

no merecen acaso reconocimiento o reparación usted no ha planteado eso jamás

creo que está claro no se trae el franquismo ahora

es que hay muchas víctimas del franquismo hay muchas víctimas de la dictadura que están vivas hay muchos familiares de asesinados

a sus familiares hay procesos judiciales abiertos hay procesos judiciales abiertos no en españa desgraciadamente sino en otros países a los que desde algunos ámbitos del estado no se pone facilidades más bien al contrario por lo tanto

justicia y reparación contra sus víctimas efectivamente señor semper usted lo ha dicho

enterrar la españa negra y nosotros no queremos enterrar la euskadi

queremos leer la historia queremos hacer memoria queremos reconocer y reparar a las víctimas cosa que no se hizo en el año setenta y ocho

en argentina por ejemplo tienen que abrirse procesos contra violadores de derechos humanos contra torturadores graves cuyas víctimas no han recibido

atendidas bajo los principios de verdad justicia y reparación por lo tanto no

el objetivo es claro construir la memoria de todas las violaciones de derechos humanos en euskadi y construirlo como garantías de no repetición es verdad que nosotros hemos aprobado la ley de víctimas del terrorismo en el estado propone el centro moral de las víctimas del terrorismo y más usted apuntaba el museo de la paz de gernika

tantos y tantos puntos de espacios de memoria que existen en euskadi

como en chile que tienen un centro memorial un instituto de derechos humanos

que todavía está terminando de pasar la página de una historia dramática negra de violaciones de derechos humanos y porque hay que hacerlo leyendo todas las páginas de esa historia para que los

los sufrimientos padecidos no se vuelvan a repetir por eso

presentamos esta proposición no de ley porque queremos que no se vuelvan a repetir eskerrik asko iturrate jauna

señor semper cuestión de voluntades eta muestra su voluntad de desarme mientras que el gobierno de su partido se jacta

de la violencia y de las vulneraciones de derechos civiles y políticos en este país pregunte en la calle pregunte incluso a la sociedad a la masa silenciosa

que detiene a dieciocho activistas de derechos humanos de herrira

que hoy en día mantiene a dieciocho familias en vilo sobre el trato

sufriendo sus familiares señor ares nos habla de rescribir la historia todavía no está cerrada lamentablemente todavía la historia de vulneraciones de agravios en este país no está cerrada cómo escribirla

relator relator único le tengo que decir es también responsable

filosófica de una responsabilidad retórica una responsabilidad etérea responsabilidad directa

no es cierto que aquí comience nada no es cierto señor ares señor iturrate ni mucho menos

durante años y no sé si se ve reflejada en este proyecto de instituto los datos que se agolpan en mi memoria y que no puedo olvidar

en los asientos en los censos en las infraestructuras electrónicas de este instituto porque eh bildu

reconoce busca reparación busca rehabilitación busca las garantías

absolutamente todas las víctimas de todas las violencias

hoy hemos arrancado hablando de un instituto de la memoria con imperdonables olvidos orain dela gutxi jaurlaritzak aurkezten zuen txosten hau

berdin tratatzeko eskubidea iturrate jauna la nación que pierde la memoria deja de ser una nación y se convierte en una mera colección de personas

con los partidos democráticos que han firmado esta iniciativa con los partidos democráticos no quiero entrar en polémicas únicamente reincido e insisto en los argumentos creo que esta proposición de ley este proyecto

no es en absoluto lo que euskadi necesita para solventar los graves problemas que tiene y en concreto

de convivencia como consecuencia de que existe eta y de que estos señores que no son demócratas siguen justificando

no es el instituto en absoluto que necesita euskadi para solventar los problemas de hoy no del siglo pasado los de hoy y creo que es una grave equivocación

es ciertamente curioso por otro lado que dos partidos políticos que condenan todas las dictaduras y todas las vulneraciones de derechos humanos como somos el partido popular y upyd rechazan esta iniciativa el único partido político no democrático es decir eh bildu el único partido político que no condena a eta se suma a ella esto también debería creo hacerles pensar a ustedes qué es lo que se está haciendo mal en euskadi para que esto finalmente sea así

quedan fuera de este acuerdo un acuerdo que supuestamente es para garantizar la convivencia

de derechos humanos y todas las dictaduras como el partido popular y upyd junto obviamente a ustedes partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi sin embargo quedan fuera de este acuerdo y votan en contra de esta iniciativa y un partido político antidemocrático como eh bildu que está incumpliendo flagrantemente la ley de partidos a día de hoy porque siguen sin condenar a eta sin embargo da el a esta iniciativa hoy vuelve a quedar

vuelve a quedar demostrado que en euskadi lo que tenemos que hacer los demócratas unidos es defender el estado de derecho que es la mejor manera de defender la convivencia nos pusiéramos todos los demócratas de acuerdo en defender el estado de derecho y defender la convivencia mejor nos iría esa es una asignatura pendiente
y espero que en el futuro pueda darse nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna eta amaitzeko

gracias señora presidenta señor arzuaga voy a empezar por usted

de desarme si somos incapaces de ponernos de acuerdo en la memoria histórica de hace dos años

cómo vamos a ponernos de acuerdo con estos señores sobre lo que ha sucedido en euskadi a lo largo de treinta y tantos años

eta ha sido derrotada por el estado de derecho eta ha sido derrotada por la sociedad vasca

eta ha sido derrotada porque las leyes funcionaron y se aplicaron eta ha sido derrotada porque los jueces hicieron su trabajo eta

eta ha sido arrinconada acorralada y derrotada y la mentira no va a ser aceptada por esta sociedad

porque si no aceptamos esa mentira en virtud de la cual eta decía matar en nombre de todos los vascos

que eta decía que asesinaba en nombre de todos los vascos hoy no vamos a aceptar tampoco la mentira de que todos tuvimos responsabilidad en que eta asesinara no es cierto señor arzuaga no tuvo la misma responsabilidad el que me quiso asesinar a mí que yo

no tuvo la misma responsabilidad usted que justificaba políticamente los

que el resto de esta cámara que nunca justificamos ningún tipo de atentado de asesinato y de terrorismo

es inaceptable que usted insista en ese discurso en esta cámara es inaceptable y no podemos ir de la mano con estos señores a ningún sitio mientras mantengan esos discursos no es que no lo podamos aceptar políticamente

que quiere construir un futuro mejor de lo que ha sido el pasado y se ríen porque les hace gracia porque nos llevan a su terreno porque nos toman el pelo

cuando ha sido derrotada no podemos seguir permitiendo que nos tomen el pelo porque señor ares y señor iturrate

de que para diluir responsabilidades lo enmarañan en el franquismo en la guerra civil y nuestro problema

hoy nuestro gran drama como sociedad es que hay vascos y no son pocos

tiene justificación hoy hay vascos que creen que eta tuvo justificación hoy hay vascos que van a aprovechar

para decir que eta no se tiene que disolver que no tiene que pedirnos perdón a los vascos por lo que nos han hecho sufrir

cuándo les ha importado a ustedes la voluntad popular en la puñetera vida los vascos les hemos pedido a lo largo de treinta y tantos años que nos dejaran en paz le hemos pedido a eta que nos dejara de asesinar de extorsionar de condicionar la política vasca y eta miraba para otro lado y ustedes con ellos miraban para otro lado

no les ha importado nunca la voluntad de los vascos nunca nunca

porque si les hubiera importado la voluntad de los vascos ustedes se hubieran sumado a nosotros al resto de demócratas

eta ha sido derrotada y lo mismo que ha sido derrotada eta militarmente van a ser derrotadas no les quepa la menor duda por el estado de derecho las ideas que ha defendido eta no les quepa la menor duda muchas gracias

va a permitir usted que me llame fascista semper jauna eskerrik asko

a un parlamentario absolutamente democrático esto es inaceptable esto no se puede

que ante este atentado a la dignidad de un parlamentario le ruegue que retire la expresión fascista

de abstención efectivamente explicación de voto no no participaré en el que usted me diga
a favor o en contra pero en el que usted me diga pero

barrio jauna no hay un turno a favor y en contra y uno de abstención participa

en el turno a favor o en el turno en contra sino explicación de voto que tendrá cinco minutos es por
dejar que los demás tengan el tiempo suficiente participaré en el de
turno en contra pero a los efectos del tiempo nada más muchas gracias bien maneiro jauna zuk non parte hartu behar duzu